muchas gracias señora presidenta con su permiso desde el escaño
para agradecer el acuerdo y como he dicho antes ahora nos toca estar

que le hemos puesto en la aprobación de esta enmienda de transacción

decirle al señor arzuaga por no firmar con usted

y una pataleta y me llama infantil dice que

yo no le llamaría infantilismo yo le llamaría parlamentarismo con principios

mediación y de resolución de conflictos usted tiene pendiente un proceso de mediación con la convivencia y con la democracia señor arzuaga y mire era mi moción

mi misión y mi objetivo era conseguir la mayoría suficiente para aprobar esta moción

se ha conseguido su posición es irrelevante para mí muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

zure baimenarekin solo una actitud política infantil puede justificar que no se busquen apoyos cuando los había solo el pretender que se quiera pasar una iniciativa que podía concitar la resolución univoca de la cámara es decir

en el ámbito del derecho de mediación por los profesionales por las asociaciones y por las personas que se pueden beneficiar de él yo no sé si hay mucha gente que nos está viendo en esta cámara pero desde luego se podría llevar las manos a la cabeza de

el traer un tema de mediación para que aquel que piensa distinto o aquel en el cual en otros temas

abierta cierto no puedan llegar a un acuerdo en una materia además que es meramente declarativa

la propuesta que ustedes han transado y la única parte que tiene en cierta manera solicitar algo

estudio todo lo demás es mera declaración y yo tengo la idea tengo la idea de parlamentario que a este parlamento le interesa hacer decisiones univocas para mandar un mensaje a toda esa gente que está trabajando por esta cuestión es por eso que le he dicho y lo mantengo que me parece que es

de mediación cuando está usted haciendo absolutamente lo contrario de lo que dice está practicando absolutamente lo contrario

que bien que se va a retomar los programas los proyectos pilotos que ya se hicieron en su momento no oiga

lo que le preguntábamos al consejero en relación a lo que pensaba hacer con esto la respuesta que fue que nos dio en enero de dos mil catorce

los servicios de mediación mercantil y social a en el segundo trimestre del dos mil catorce y estamos finalizando

se van a hacer sino que se van a retomar programas piloto

hemos rebajado la petición inicial de nuestra enmienda de totalidad fundamentalmente para que esto sirva para algo

presente el gobierno un estudio en relación con la mediación que sea serio y no simplemente se limite a decir no lo tomaremos en consideración la puesta en marcha otra vez de un proyecto piloto

porque yo me voy a poner fina porque estamos también mediando y en este caso no quiero

tengamos una resolución un acuerdo de esta cámara que haga que el gobierno haga algo en relación con este asunto porque en año y medio de gobierno no ha hecho absolutamente nada y es el objetivo segundo
de su programa de gobierno gracias eskerrik asko gallastegui andrea zorrilla jauna

eserlekutik no tenía previsto intervenir pero bueno ya que la señora gasllastegui por alusiones yo lo que decía y en esto quiero ser serio como usted dice que hay que ser serio quiero ser serio lo que decía es que de acuerdo

hacer un estudio en el plazo de seis meses de la posible implantación y desarrollo

y le decía que además además de ese plazo de que en seis meses se haga el estudio tal y como se le contestó por escrito a sus preguntas

los servicios de mediación mercantil y social una cosa

además atendiendo a sus preguntas y a sus planteamientos se le contesta o se le indica que

se iniciaron por el gobierno socialista y que se suspendieron por su escaso resultado y digamos por no haber motivos presupuestarios por no haber consignación presupuestaria y como decía

la señora consejera en aquel momento socialista se trata de aprovechar hacer un aprovechamiento lo más eficiente posible de los recursos existentes eso es

presidenta señorías garoña de nuevo en este parlamento probablemente

como asunto será una de las carpetas que en cualquier despacho de cualquier grupo tenga más papeles

tratamos fue el seis de febrero de este año creo que en aquella que se convirtió en una enmienda transaccional firmada por el partido nacionalista vasco bildu y nosotros se abordaron bastantes más aspectos

de volver a tratar en estas circunstancias este asunto o en este tiempo este asunto

lo que en su día era una sospecha yo recuerdo que aquel seis de febrero uno de los argumentos que utilicé
es que el gobierno de españa isiltasuna mesedez

que precisamente había sido la política de ese gobierno la que había llevado a hacérselo pensar a las empresas que explotan actividad fundamentalmente una política fiscal que después se vio también sobrepasada por una política medioambiental y por lo que pasó con fukushima y con las nuevas exigencias europeas todo ello significaba un desembolso de capital extraordinario que les hacía

que aquello no era rentable y fruto de esa política de este mismo gobierno que está hoy

del país ambas empresas nuclenor decidió que

bien de entonces a aquí como acabo de mencionar sospechábamos que el gobierno estaba tratando de desdecirse de aquellas decisiones que había tomado y que tenían un coste económico que el gobierno por un empecinamiento político iba a poner la alfombra a

para que pudiesen animarse a reactivar esta actividad y efectivamente esto sin tener todos los datos en la mano es lo que ha venido ocurriendo y en este momento ya endesa e iberdrola han pedido la reanudación una

nada más y nada menos que diecisiete años lo cual colocaría

que en su día estaba prevista para una explotación de cuarenta años en sesenta aproximadamente y que además tardaremos tiempo en saber si incluso desde el punto de vista de la seguridadesto es posible entre otras razones porque aproximadamente se necesita un año para que se pueda conocer el aspecto de la seguridad y de las nuevas exigencias que sobre seguridad haya a este respecto bien así las cosas de nuevo

provoca un desafío sobre este tipo de energía en una sociedad que ya ha pagado desde el punto de vista social la servidumbre de una actividad energética que es altamente peligrosa que puede tener

porque no estamos planteando que una central nuclear por una idea de política energética que lleva cinco años se cierre o que lleva diez años se cierre estamos planteando que una central nuclear que ya ha cumplido con su vida útil y que ya el gobierno anterior

decretó su cierre simplemente que se cierre que se le dé un tratamiento a los residuos y que tan lógico como lo que demanda la inmensa mayoría de la sociedad que es que vayamos avanzando hacia las energías renovables y que es que vayamos dejando a las siguientes generaciones una sociedad un planeta menos contaminado y con una situación mucho más razonable medioambientalmente a lo que significa el progreso

el progreso y la conciencia que hay en relación con las energías es una central nuclear que no se necesita es una central nuclear que no aporta nada una producción energética que no sirve en todo caso es una central nuclear que el único objetivo que puede tener es el de producir unos beneficios para quienes la explotan

fuera de esos beneficios para la explotación si medioambientalmente no tiene ningún futuro si socialmente no se quiere si energéticamente no se necesita no hay ninguna otra razón

de un gobierno que quiere doblegar una posición social bastante incluso política bastante acusada y bastante mayoritaria simplemente por su cariño por su querencia

centrales nucleares donde no es necesario que las haya este es un problema netamente político porque aunque endesa

desarrollen una actividad que puede gustar a unos y puede disgustar a otros la realidad es que en estos momentos ninguna de las firmas empresariales que está en la explotación de la energía nuclear o que quiere

por sí sola podría hacerlo no es un negocio que podría montar tiene que ser una concesión

que bajo el criterio político por lo tanto nosotros hemos querido situar la responsabilidad y cargar la responsabilidad en quien la tiene que es la política por eso estamos en este parlamento

invitar a este parlamento a que de nuevo ratifique una posición política a este desafío y a esta provocación que significa políticamente volver a hablar de la reapertura de una central que tendría que estar absolutamente cerrada por lo tanto este es el planteamiento y este es el contenido de la iniciativa este es el objetivo de la iniciativa a un nuevo paso a una nueva vuelta de tuerca del gobierno de españa para forzar como sea que la central nuclear

la posición política de una cámara que representa a la ciudadanía vasca

abrumadoramente mayoritariamente se ha mostrado en contra de esta energía y de esta iniciativa y que necesita volver a poner en valor volver a reafirmar volver a llamar la atención sobre esta barbaridad que se quiere hacer esta es una iniciativa

muy poco contenido porque se trata simplemente de reafirmar

alguna enmienda de algún otro grupo en concreto el grupo nacionalista ha planteado una serie de cosas una de ellas se ha recogido en una enmienda transaccional

se someterá a votación desde nuestra iniciativa es ese primer texto nuestro con ese otro texto que se incorpora de la enmienda que planteaba

de nuevo una vez más esa abrumadora mayoría que se ha manifestado en otras ocasiones por este parlamento en representación de la ciudadanía vasca manifieste que en total desacuerdo totalmente en contra que pedimos el cierre definitivo de la central nuclear que no se juegue con la expectativa de su reapertura

que está solo en manos de la política y que por lo tanto es lo más lógico y lo más razonable
en otra cámara política sea también donde se de respuesta a este problema que es político y que es ciudadano muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

porque señores del pnv y señoras del pnv iberdrola es garoña

sus ingresos económicos poniendo en funcionamiento un reactor nuclear obsoleto de araba iberdrola es la empresa propietaria del cincuenta por ciento de garoña que busca el máximo beneficio económico propio a base de poner en peligro la seguridad y la vida de miles de alaveses y alavesas a base de depositar en el medio ambiente toneladas de residuos radiactivos

no podemos poner solo el foco en el gobierno del partido popular el partido popular tiene su responsabilidad y tendrá que responder por ella pero quien solicita la reapertura es nuclenor

pedíamos que se revisaran todos los contratos que la administración pública vasca tiene

para utilizar otras empresas a la hora de contratar el suministro eléctrico revisar y analizar las vías legales que se acabaran con esas contrataciones que se rompieran esos contratos que nos lo podía pedir el cuerpo pedimos que se revisen y se analicen las vías legales lo mismo

favorable de euskal herria bildu y el partido socialista y la abstención del partido nacionalista vasco esperemos que hoy cuando menos se abstengan también esos dos partidos bai

se sitúen por encima de la seguridad de miles de vecinos de dicha empresa no es bueno que unas instalaciones nucleares con más de cuarenta años de funcionamiento prolonguen su actividad hasta los sesenta años

no escuchen la voz de las juntas generales de álava de decenas de ayuntamientos vascos del gobierno vasco y del ochenta y ocho por ciento de los votos de este parlamento como decíamos antes como decía el señor prieto es un clásico lo hemos tratado y lo hemos votado

y es difícil decir algo nuevo a cerca de garoña lo que hace unos meses parecía una esperanza para nos pocos que se tradujo al final que existían posibilidades de que el ministerio de industria pusiera las cosas difíciles para reabrir garoña

que los dueños de nuclenor en la reapertura de esta ya vieja ya central nuclear se ha tratado de un sainete perfectamente dibujado por algún estratega del marketing

de una ya oxidada central nuclear en contra de la opinión de la mayoría de quienes convivimos geográficamente con ella y el de la mayoría del pueblo vasco no estamos hablando de que sean cuatro o cinco antisistemas los que piden el cierre de garoña sino lo que hemos pedido ayuntamientos parlamento gobierno empezaron presentando a el ministro de industria como el látigo de las empresas eléctricas y parece

la reapertura de la central nada de extrañar en un país donde quizás mandan más

y al final nos hemos enterado de que el único motivo de cierre podría haber sido que la misma empresa concesionaria

entender que la explotación no le iba a salir muy rentable

y a las empresas explotadoras que era la reapertura de la central una de las empresas explotadoras realizó una campaña de publicidad hace escasos meses en la que presentaba a sus accionistas

que declaraban cómo con los dividendos de sus acciones de dicha empresa podían pagar la carrera de sus nietos las vacaciones de verano y demás creo que se trataba de seiscientos mil accionistas y no es justo como empezábamos diciendo

a lo sustancial de la petición del cierre de garoña que no es otro aspecto que de la seguridad me escucharán citar más que una vez la cifra esta de trescientos mil personas hoy como otros días no tenemos que hablar ni de las tarifas eléctricas ni de la energía nuclear en general tenemos que hablar

en particular hoy queremos cerrar garoña y nuestro único argumento es este

y amortizada vida de sus instalaciones no hemos jugado nunca con la truculencia ni con el catastrofismo porque no la deseamos no queremos ni siquiera imaginar las consecuencias de un accidente nuclear en garoña pero tenemos serias dudas acerca de la posibilidad de evacuación

que viven cerca para no imaginar estos desastres nos basta además con las imágenes de harrisburg chernobyl y fukushima que hablan por sí solas yo creo que quien retenga en su retina las escenas de los habitantes de los alrededores de fukushima su imposibilidad de volver a sus casas y sus tierras en décadas

a que garoña vuelva a funcionar algún día hasta cumplir los sesenta años el ligero incremento de los dividendos de estos seiscientos mil accionistas no justifica el miedo en el cuerpo

vecinas y cercanas a garoña entre ellas los habitantes de vitoria gasteiz

y estamos a una distancia en línea recta de cuarenta y cuatro kilómetros trescientos ochenta y cinco metros con una orientación y velocidad de los vientos que harían posible

se presentara en la calle dato en apenas dos horas y quién podría evacuar una ciudad como vitoria gasteiz en dos horas me imagino que sería completamente imposible en la pnl socialista se instaba al gobierno de españa a que no autorizara la nueva licencia

a abrir garoña pues el hecho de que le pidamos que por favor

yo creo que en eso somos pesimistas y creo que el permiso se va a conceder

hemos añadido que solicitaremos el amparo de la comisión europea ante una posible reapertura de la central un amparo que supervise el procedimiento de concesión de dicha licencia y que asegure el cumplimiento de las exigencias de seguridad impuestas después

se nos puede acusar de pesimistas porque en una misma enmienda votamos el pedir que lo cierren

de control europeo señor maeztu nosotros no despejamos ningún tipo de balón tenemos

pero tenemos diferente estrategia nosotros no calificamos la suya la entendemos

y nos abstendremos ante la votación pero la estrategia es diferente la nuestra es otra pero insisto lo que importa aquí

habitual de votos en contra de garoña es que estamos todos en contra de garoña es decir que la estrategia y que el camino no nos despisten del voto útil en este caso que es intentar

decía que no quería hacer un discurso catastrofista pero ha hablado de vieja central nuclear de oxidada central nuclear de falta de seguridad evidente de evacuación de fukushima de catástrofe nuclear de miedo en el cuerpo de nube tóxica en fin estos son los adjetivos y las expresiones que usted ha utilizado señor

en el segundo turno de su intervención baje las explicaciones técnicas y los documentos que usted tenga en su poder para explicarnos por qué habla de todas estas cuestiones es decir si tiene efectivamente datos

para que usted haya venido aquí a hablar de nube tóxica de evacuación de catástrofe nuclear y de miedo en el cuerpo en el segundo turno me imagino que podrá

y nosotros vamos a defender las mismas cosas que hemos defendido hasta ahora prácticamente o básicamente son tres asuntos sobre los que cabría hablar también se puede hablar sobre la energía nuclear aunque el señor ramírez

por un lado firme enmiendas y no me refiero a la de hoy críticas con la energía nuclear y luego sin embargo diga que no hay que hablar de la energía nuclear en general si no que en concreto hay que hablar de esta obsoleta central nuclear que usted

al detalle pero cabe también hablar creo yo del debate sobre la energía nuclear y luego ya de paso le preguntaré si está de acuerdo con las afirmaciones realizadas

es imprescindible también esperamos que usted baje a la tribuna y nos explique si

debate sobre la energía nuclear el debate sobre la central nuclear de garoña en concreto como está qué futuro tiene o que se le puede exigir para que se pueda reabrir o no y finalmente y el tercer punto que es algo que nosotros hemos tratado en este parlamento

y poniendo en bastantes ocasiones el acento precisamente en esta última cuestión es decir el vodevil al que hemos asistido durante los últimos dos años y que hemos venido

se está haciendo mucha demagogia con todo lo relacionado con la energía nuclear se ha hecho de la postura antinuclear una especie de mantra en ocasiones defendida

con medias verdades o incluso con falsedades sin ir más lejos ha habido quien ha dicho que la central nuclear de garoña se cae a pedazos pero para sustentar esta opinión pues nadie ha traído aquí datos fehacientes que demuestren este hecho desde luego

se cae a pedazos y ustedes pueden demostrarlo me refiero a ustedes que son técnicos en la materia nosotros inmediatamente pediremos su cierre o

evidentemente por lo tanto y en primer lugar garantizar todas las medidas de seguridad pero ustedes han hablado aquí de riesgos inminentes para los alaveses han hablado de que la central nuclear es obsoleta han hablado de que está oxidada

han hablado de todo esto y a mí personalmente que no tengo nada en contra ni a favor de la central nuclear inicialmente pues a mi ciertamente me

en las cosas que se dicen nosotros pensamos como la consejera tapia señora tapia que la energía nuclear juega un papel importante y que sigue siendo por tanto

nosotros pensamos que un sistema de mucha energía renovable necesita una potencia garantizada de base que permita compensar los altibajos de precios y de potencia de las renovables también los picos y los valles de la demanda o los fallos de otras fuentes y ahí las nucleares cumplen sus funciones señor ramírez

o no estamos de acuerdo en esto si no son nucleares tienen que ser centrales térmicas de gas fuel o carbón que contaminan la atmósfera y dependen de hidrocarburos o carbón importado por eso a nosotros nos parece bien conservar

que hay para ese papel fundamental siempre y cuando cumplan todas las condiciones de seguridad esto es indispensable que se cumplan todas las condiciones de seguridad la opción del futuro será el aumento de las energías renovables alternativas como la eólica pero estas energías tienen aún costes elevados por lo tanto a día de hoy la energía nuclear

necesaria por eso defendimos y defendemos que la central nuclear de garoña cumpliendo rigurosamente todos los requisitos exigidos y todas las condiciones de seguridad que sean necesarias podía seguir funcionando estos requisitos no los garantizan ni los tiene que

es decir que podría seguir funcionando puede seguir funcionando si cumple estrictamente todas las medidas de seguridad y si no las cumple no este es nuestro planteamiento

al que hemos asistido durante los últimos meses y que nosotros hemos denunciado no voy a hacer un relato de los hechos pero en fin aquí ha habido chantaje a habido presiones y ha habido creación de normativa ad hoc hasta llegar a la situación

en un momento determinado pretende condicionar las decisiones del gobierno de españa nosotros decíamos aquí en sede parlamentaria

ha tratado de presionar al gobierno para poder disfrutar de determinados beneficios y privilegios y decíamos que esto a nosotros nos parecía absolutamente inaceptable pero es lo que ha terminado ocurriendo

y en concreto el segundo punto de la última enmienda que presentábamos cuando proponíamos instar

a no crear normativa ad hoc para ninguna central nuclear ni aplicar la existente de forma espuria ni a realizar interpretaciones tramposas de la normativa vigente para beneficiar determinados intereses particulares ni a conceder ningún tipo de beneficio fiscal personalizado a que no ceda ante ningún tipo de presión

siempre y en particular en este asunto con absoluta claridad y transparencia esto es lo que hemos venido defendiendo durante los últimos meses en esta

las demás que el gobierno no aceptara ningún tipo de chantaje y obviamente que se garantizara la seguridad absoluta de cualquier central nuclear y en concreto de la centra nuclear de garoña

que es por cierto básicamente lo que pretendíamos defender a través de una

por fallos técnicos en este caso de upyd pues no pudimos registrar a tiempo pero que planteaba decir lo siguiente planteábamos que este parlamento instara

y por tanto todas las inversiones necesarias como condición indispensable para que la central nuclear de santa maría de garoña pudiera si fuerael caso

haciendo respetar estrictamente en todo caso y sin trampas de ningún tipo europea de seguridad y las exigencias internacionales que es por cierto parecido a uno de los puntos que ustedes han terminado firmando en su transaccional

ustedes dicen que la central nuclear de garoña es un peligro dicen

dicen que no puede reabrirse porque está vieja obsoleta y oxidada y sin embargo en su segundo punto de la transaccional vienen a decir que ojo si se reabre que sea europa quien controle si efectivamente respeta

respeta las medidas de seguridad o no respeta las medidas de seguridad hay posibilidad de que respete las medidas de seguridad o no hay posibilidad si no hay posibilidad

que controle que efectivamente cumple las condiciones de seguridad

y añadíamos un segundo punto nosotros queremos y queríamos que este parlamento

actuación oscurantista y poco edificante del gobierno de españa en todo lo que se refiere al proceso de cierre y posible apertura de la central nuclear de garoña efectivamente porque se ha actuado mal con oscurantismo y se ha cedido al chantaje y esto es una chapuza claro evidentemente ante esta situación y ante esta chapuza pues defender determinados argumentos o defender simplemente unos argumentos

pero en todo caso yo lo he intentado en conclusión la energía nuclear sigue siendo a día de hoy indispensable y debe seguir formando parte

segundo la central nuclear de garoña cumpliría su función pero solo debe abrirse si efectivamente cumple estrictamente todas las medidas de seguridad sino no

todo el proceso que hemos vivido ha sido un proceso ciertamente lamentable caracterizado por el chantaje la trampa las presiones el oscurantismo la falta de información y la normativa ad hoc en fin esto es lo que nosotros pensamos sobre la cuestión creo que no hemos dicho nada nuevo en relación

no es el debate de la energía nuclear sí o la de la energía nuclear no

seguramente si ese fuese el debate habría otros ponentes otras intervenciones

y seguramente un resultado diferente de la votación que veremos después no sé si sería tan fácil poner de acuerdo algunas voluntades no es ese el debate de hoy

es una posición de la izquierda en absoluto los amigos de bildu en alemania los de merkel son los que precisamente han declarado la guerra a las centrales nucleares y es el gobierno de merkel el que tiene un plan para cerrar centrales nucleares

y este no es el debate de la energía nuclear este es otro debate es el debate de la central de santa maría de garoña en ese punto me gustaría empezar diciendo que

a la verdad cuando se dicen algunas cosas o descubrir cuando no se dicen esas cosas de forma veraz qué no se está haciendo

entre otras características de su actuación en los últimos años se ha caracterizado por enfrentarse a las eléctricas

es público y notorio no porque lo leamos en los medios de comunicación que lo leemos no porque sepamos que existe el debate de la tarifa energética que lo sabemos sino porque son las eléctricas

las que dicen que este gobierno les ha puesto cara se les ha puesto de frente

contextualiza bastante bien la posición que también rodea este debate de garoña pero no podemos resistirnos a tener en cuenta que los hoy valedores de la posición de que garoña es algo oxidado

y generador de nubes tóxicas tienen también alguna responsabilidad

la primera vez que yo dije que la central de garoña había que cerrarla la primera vez que yo dije en público que la central

acabábamos de ver cómo se habían ampliado el ciclo vital

la central de garoña estaría cerrada afortunadamente cerrada si precisamente aquel gobierno hubiese cumplido lo que entendemos hoy y lo que entienden los socialistas vasco hoy que era un objetivo importante

si lo que ahora dicen que piensan que me consta que lo piensan porque lo creen lo hubiesen aplicado en su momento no tendríamos este debate aquí y ni yo lo hubiese dicho como candidato a la alcaldía en su momento

ni lo hubiese dicho como alcalde de vitoria teniendo a rajoy de presidente

nuclear de garoña debe cerrarse ya así de contundente no tendríamos ese debate tampoco tendríamos ese debate si precisamente

y hago así corríjame señor maeztu si me equivoco en algo si seguimos

referencia a los paralelismos y a los sinónimos de

yo pondría alguno delante si iberdrola es garoña los accionistas

también son garoña y entonces kutxabank también es garoña

entonces el pnv es garoña y si tenemos al pnv que es garoña siguiendo ese símil tenemos al pnv que es garoña

pero los del pnv vienen aquí a decirnos que hay que cerrar garoña oiga pues coja el teléfono ese que conecta desde su escaño

oiga que me dicen que somos garoña o lo somos o no lo somos también aprecio una importante contradicción en la postura del grupo nacionalista

la posición de bildu es del todo rocambolesca lo voy a decir así de suave ese papelito que ha sacado aquí a última hora es su factura

yo no es la factura de iberdrola es de una cooperativa eléctrica que no tiene nada que ver

porque usted es uno ahora me gustaría saber de los demás parlamentarios dos van a seguir levantando la mano los podemos contar tres cuatro alguien da más cuatro

de veinte de eh bildu han tomado la iniciativa de hacer en la práctica

cuatro de veinte los que no están posiblemente estarán firmando el contrato nuevo y los que están leyéndose el libro estarán mirando señora mintegi las condiciones de lo pasa al romper el contrato

la enmienda de hay que romper hay que romper los contratos a día de hoy los que lo pregonan de momento cuatro de veinte no está mal

pero vamos a continuar ya que estamos hablando de la ejemplaridad de los que se sientan aquí pero hablan de la casta la diputación de gipuzkoa cuántos contratos ha roto con iberdrola porque me imagino yo que los

tendrán algo que decir también tendrán algo que decir o no se puede venir a decir las administraciones vascas tienen que romper con

se puede decir eso pero aquí nosotros en la diputación pues en fin esto

sí o no pero lo digo porque señor maeztu para ser minimamente creíble no hace falta salir aquí diciendo que no sé qué de la casta de tal que por cierto

es decir si uno se cree lo que piensa porque es muy duro decir lo que se piensa en cualquier lugar ante cualquier foro

con el corazón en la mano usted cree de verdad lo cree alguien de bildu de los cuatro entre veinte que han roto el contrato con las empresas garoña y el resto

diputado no sé si viene de romper o no pero en todo caso igual le sube la media pero en todo caso

usted cree que entendiendo como yo creo que usted

que se le puede pedir a los ciudadanos se les puede decir a los ciudadanos que

unilateralmente los contratos con una empresa con la única consecuencia de que hay que indemnizar a esas empresas porque tienen el derecho

que han ganado públicamente en un contrato según nuestra legislación está diciendo eh bildu sí o no que hay que detraer de las partidas del señor gatzagaetxebarria una cantidad

a las ayudas sociales o a las prestaciones de lanbide dedicarlo a colocarlo

tener una indemnización pagado de las arcar públicas es decir del dinero de todos los vascos para que esas

puedan dar cumplimiento a la ruptura también unilateral por parte del gobierno porque usted si es verdad que lo ha hecho y no lo pongo en duda usted

usted sabrá lo que hay pero la administración pública

se vincula también con ella en el cumplimiento durante un período de tiempo y con unas condiciones y romper unilateralmente un contrato que ha ganado una empresa de forma pública transparente en un contrato de adjudicado según un sistema de contratación pública

entonces se le ha olvidado en su enmienda esta que no vamos a poder votar lamentablemente se le ha olvidado decir vamos a pedir al señor gatzagaetxebarria que incorpore una partida adicional en el presupuesto para que con el dinero de todos los vascos

para que así también se vea respaldada la posición que tienen cuatro de veinte parlamentarios de eh bildu porque de los demás de momento no se sabe no contesta igual de cara al segundo turno tenemos alguna respuesta adicional o crece el número

perdona que se lo diga no lo son porque los hechos son amores y las palabras de las lleva el viento son dos refranes muy castellanos pero yo creo que son también

muy fidedignos de lo que está pasando en esta cámara con su grupo

a manifestar que está a favor del cierre de la central nuclear de santa maría de garoña

parlamentario y de su propio partido para manifestar tal cosa sin embargo algo que a mí me ha parecido en las ocasiones que lo ha hecho obedecía a un convencimiento hoy me ha creado una duda porque si de verdad usted está por el cierre de la central nuclear de santa maría de garoña

una intervención cargada de una cierta frivolidad probablemente que denota

da las razones de por qué está convencido cuando uno está jugando al oportunismo político y al quedar bien a jugar a varias bazas a la vez

pues se desliza por terrenos que la verdad no aportan absolutamente nada si usted está a favor de que se cierre la central nuclear de santa maría de garoña supongo que será porque ya

porque supone un riesgo porque tiene unos residuos porque la sociedad que está a su alrededor ya ha cumplido con una servidumbre

y por lo tanto sería razonable que usted hiciera una defensa creíble de su posición política pero en mi opinión ha hecho una defensa increíble de su posición política efectivamente aquí no estamos discutiendo la energía ni cuál ha sido su historia ni la contribución

a la economía a lo que fuere no estamos discutiendo eso efectivamente no es un debate sobre energía nuclear sí o energía nuclear no es un debate sobre la central nuclear de santa maría de garoña

si la central nuclear de santa maría de garoña y también esto le puede servir al señor maneiro fuera una fuente de energía necesaria e imprescindible probablemente ni endesa

curiosamente esta central nuclear solamente se cierra cuando

una falta de expectativa de lucro es decir cuando se calcula esta central nuclear tiene que invertir ciento cincuenta millónes de euros en modernizar sus instalaciones en asegurar sus instalaciones y cuando se asegura que tiene que pagar una cantidad similar por el tratamiento de los residuos radiactivos por

impuesto que lo hace para la energía nuclear el gobierno del señor rajoy cuando ambas cosas coinciden cuando a la cuenta de explotación se le tiene que meter esos trescientos millónes de euros es cuando la central nuclear

cuando anuncia nuclenor el cese de la actividad el que la tiene que cerrar pero la tiene que cerrar porque efectivamente no hay expectativa de beneficio para quienes están explotando esa central es decir quienes están explotando la central no están preocupados por la seguridad

porque la ciudadanía vaya a darle al enchufe y no tenga corriente no no porque además todo el mundo sabe que la aportación energética ya ha sido sustituida por otras fuentes de energía que no es necesario si la central nuclear de santa maría de garoña cierra no deja de haber energía para las necesidades alavesas vascas burgalesas etcétera

no se ha necesitado esa fuente de energía nadie la ha pedido nadie la ha reclamado

lo único que ha pasado es que quienes la explotaban perdían su

que es el suyo que es el del señor rajoy que lo ha hecho tramposamente que no lo ha explicado todavía a la sociedad que les ha hecho un compromiso de que ya veremos qué pasa con la seguridad y con las inversiones que necesita en la seguridad que ha planteado a la vez

ya lo resolveremos para que ustedes no tengan que pagar y en realidad el único negocio que hace su gobierno con la sociedad española con la sociedad vasca con la sociedad castellana el único negocio que hace es decirles

sigan ganando dinero yo tomo estas medidas que ellos abran la central y ya no importa si hay problemas de seguridad

todo absolutamente todo pasa a un último plano da exactamente igual

es recomponer el beneficio de esas empresas por una actividad que ya no la quiere nadie y que no la necesita nadie responda de eso responda de lo que hace su gobierno

pero en estos momentos hay un problema usted es el alcalde de vitoria además de ser un parlamentario y tiene un problema con su sociedad con su ciudadanía tiene un problema y tiene que dar la cara pero tiene que dar la cara no de su posición amable y simpática tiene que dar la cara de lo que hace su partido y lo que hace su partido y lo que hace su gobierno es absolutamente contrario a los intereses de este parlamento a los intereses de la ciudadanía vasca y además es contrario también por lo que veo a los suyos

nire zalantzak ditut bozka hori eraginkorra izango den ala ez y al señor maroto como él decía con todo el respeto

el problema de venir como alcalde al parlamento de vitoria es que a veces se le olvida ser parlamentario

de cara a los contratos que tiene este gobierno y las administraciones con iberdrola no encontrará en nuestra

la palabra romper los contratos sino revisar los contratos y ver cuáles son las medidas legales para contratar con unas empresas que no tengan nada que ver

y usted ha dedicado más de la mitad de su intervención a hablar de romper contratos a hablar de indemnizaciones que puedan surgir cuando no

se ha aprobado y espero que usted haga caso a la mayoría de lo que dice su corporación pero que usted miembro del partido popular que yo sepa nos hable de coherencia en el debate de garoña cuando las dos veces anteriores que eso se ha debatido aquí usted ha votado diferente a lo que dice su partido cuando usted viene aquí a hacer un debate nimby

como alcalde y quiero conseguir los votos eso es un debate nimby

real y sincero que usted nos hable de coherencia

del discurso ecologista no si usted ha citado en alemania

para el año dos mil treinta un plan de desmantelación de todas las instalaciones nucleares en italia mediante referéndum una palabra prohibida en el reino

iniciar un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares

que deben ser más listos que nadie ahí no hay una ley ad hoc negociada en los despachos con las eléctricas para

de impuestos medioambientales que lastrarían e impedirían que se volviera a abrir garoña

un reactor nuclear con fecha de caducidad a los cuarenta años y que tiene cuarenta y nueve años de vida aquí a las puertas de araba a las puertas de su ciudad eso es coherencia lo suyo es coherencia que pertenece a ese partido que hace esa legislación eso es la coherencia suya

de cuántos parlamentarios de euskal herria bildu tienen contratos con goiener

señor maneiro me abruma usted con sus preguntas un poco más y me hace un cuestionario y me asombra con su demagogia bueno esto último no porque siempre es más de lo mismo

y sin embargo la antiprueba que funciona bien es un acto de fe o sea usted no da ninguna prueba de que está bien y simplemente nos dice demostrarnos que está mal pues mire la demostración más simple es que tiene cuarenta años que la tecnología es de los años sesenta y aunque la hayan recauchutado año a año pues evidentemente sigue siendo una tecnología pasada de moda y vieja usted sabe lo que es el penbu

si no sabemos las cosas el penbu es el plan de emergencia nuclear de burgos

si una empresa pone un plan de emergencia y todos los años hace simulacros de evacuación de escuelas de pueblos y demás quiere decir que hay algún presunto peligro yo cuando he hablado de nube tóxica he hablado de presunta nube tóxica de hipotética yo nunca lo he dado porque nadie lo quiere yo simplemente decir no quiero ni truculencias ni catastrofismos

más o menos ya viendo eso ya le mandaremos un video del después de fukushima

no hace falta que le hagan muchas pruebas de cómo está la central de garoña me decía también como pregunta trampa el tema de la consejera tapia yo soy el primero en decir que hoy aquí no venía a hablar ni de tarifas eléctricas ni de energía nuclear en general yo soy antinuclear pero entiendo que haya gente que piense de otra forma hoy hemos venido a hablar no de la energía nuclear sino del cierre sí sí sí del cierre de la central nuclear

señor maroto me esperaba de usted un argumento intelectualmente más brillante pero eso de decir siempre lo de un cuatro por ciento de

kutxabank es iberdrola kutxabank es pnv luego pnv es garoña

y también le puedo decir a usted lo siguiente cuando en la caja vital donde también tenía cierto mando el partido popular en álava se integró kutxabank ustedes también podrían haber dicho oiga que en la caja vital no se integre kutxabank es iberdrola kutxabank es garoña y el pp a través de la caja vital también va a ser garoña es decir es un argumento

que al ser la quinta vez que se vota en cinco años esto más que útil es bastante inútil yo me refería al voto útil a la hora de sumar mayorías a la hora de que todos de que el ochenta y ocho por ciento pidamos lo mismo y la mejor demostración de que no es un voto útil

vamos a pedir que la cierren pero rápidamente decíamos pues oiga si no la cierran vamos a intentar que haya un control europeo que también decía maneiro que es una cosa incongruente no es incongruente simplemente

todos contentos pero por si acaso no lo cierran vamos a intentar que si la reabren haya una comisión europea

está vieja está oxidada en fin habla de nube tóxica habla de catástrofe nuclear habla de fukushima habla de todo esto y luego me dice no señor maneiro

si usted ha dicho que está fatal que se cae a pedazos usted tendrá que demostrar con apuntes técnicos efectivamente que eso es así yo no soy un técnico en la materia yo no sé si la central nuclear de garoña

lógicamente tiene que cumplir los máximos requisitos de seguridad por supuestísimo que sí eso lo hemos dicho siempre si los cumple adelante y si no los cumple que se mantenga cerrada esto es lo que nosotros décimos

y dicen ustedes que no hemos venido a hablar de la energía nuclear sin embargo en la transaccional que ustedes han firmado sí

en coherencia con los reiterativos pronunciamientos de las instituciones vascas todo lo demás y ha habido pronunciamientos en relación a esta cuestión en las que ustedes expresamente han dicho que la energía nuclear es una energía potencialmente insegura de por vida y porque la sociedad apuesta por energías renovables ustedes por lo tanto han hablado de energía nuclear y esto es lo que yo he hecho en mi primera intervención hablar también de energía nuclear

la consejera tapia de si efectivamente a día de hoy la energía nuclear es importante y es indispensable y efectivamente lo es y además

lo cierto es que decían también que la sociedad actual apuesta por energías renovables es decir como si las energías renovables pudieran sustituir a la nuclear es decir ustedes han venido hablando reiteradamente de energía nuclear y me parece bien y yo también lo he hecho no sé por qué en sus segundas intervenciones nadie quería hablar sobre la cuestión y únicamente se quieren centrar en la central de garoña hay asuntos interesantes en el segundo punto de la transaccional que ustedes han firmado pues ciertamente se hace referencia a la seguridad

se asegure que la comisión europea asegure el cumplimiento de las exigencias de seguridad impuestas después del accidente de fukushima ante la posibilidad de concesión de una nueva licencia es decir por un lado dicen que esta central nuclear no cumple ningún requisito

y está como está que se cae a pedazos y sin embargo dicen no pero vamos a preguntar por si acaso lo que dice la comisión europea y además es contradictorio

del grupo socialista donde expresamente se dice ningún informe técnico puede avalar la seguridad de su continuidad sin embargo luego piden un informe

contraindicaciones y contradicciones en lo que ustedes han firmado y en sus discursos

totalidad pero desgraciadamente ustedes no lo han incluido en su enmienda de transacción cuando piden que la composición del consejo de seguridad nuclear

en la materia me parece muy interesante de lo mejor que se ha escrito en relación a esta cuestión en el debate de hoy y en las enmiendas que se han presentado sin embargo curiosamente ustedes esto

la despolitización del consejo de seguridad pero sin embargo ustedes parlamentarios que no conocen el asunto que no tienen conocimientos técnicos sobre la cuestión sí dicen al gobierno de españa que no tiene que admitir su reapertura es decir el consejo de seguridad no puede decirlo porque está politizado sin embargo ustedes supuestamente

la reapertura en definitiva nosotros qué es lo que décimos que la energía nuclear a día de hoy es indispensable y ustedes lo saben perfectamente

la central nuclear de garoña podría reabrirse si efectivamente cumple todas las condiciones de seguridad todas y cada una de ellas y si no las cumple

si cumple los requisitos puede reabrirse o no nosotros pensamos que efectivamente si es insegura como ustedes dicen

si está vieja si se cae a pedazos si es un peligro público si todo eso que ustedes dicen es verdad nosotros pensamos que evidentemente no puede reabrirse pero eso ustedes no lo han demostrado ni siquiera pueden decirlo no tienen conocimientos técnicos suficientes

los técnicos y es también otra de las cosas que nosotros pedimos por lo tanto más rigor y menos demagogia

señor ramírez escudero le voy a hacer caso

voy a seguir su consejo hay que salir aquí como ha dicho con alguna cosilla más y la verdad es que

lo queremos hacer un anuncio y un anuncio

el grupo popular el partido popular del país vasco por primera vez en esta cámara va a votar juntos para pedir el cierre definitivo de la central nuclear de santa maría de garoña las posiciones fáciles

no son tan fáciles cuando resultan incómodas como seguramente va a resultar incómodo también

la última vez que hemos hecho manifestación de esto lo hemos hecho precisamente no en un corrillo en la sede de génova mandando una carta amable a no sé quién la última vez he tenido la oportunidad de decir no a garoña ha sido en vitoria delante del ministro soria y con una testigo

para usted también que es la consejera tapia delante de ella

que reconsiderase su posición y le advertí que la sensibilidad de los ciudadanos

es diferente es una sensibilidad como la que trato de defender desde el primer día hoy exactamente lo que va a hacer el grupo popular en el parlamento vasco hoy también

esa impresión lo difícil no es decir las cosas es creérselas y actuar siempre consecuentemente y también quiero decir una cosa quiero agradecer muy profundamente al grupo al que pertenezco al grupo popular vasco la posición que van a tomar hoy

muy bien en la calle es una posición que se entiende especialmente bien en álava y en vitoria y también lo quiero decir